inhibe una responsabilidad colectiva en el sostenimiento de la vida y más aún establece una amenaza constante sobre esta que termina resolviéndose malamente en esperas feminizadas e invisibilizadas

handiaren aurrean neurriak hartzea ezinbestekoa delako es importante resaltar y tener en cuenta que el empleo doméstico en régimen interno

y seguiremos trabajando en este sentido nos manejamos en la hipocresía sabemos que esas mujeres están trabajando empleadas en este sector

que estén en este sector porque con su presencia ayudan a resolver una parte muy importante de la demanda creciente de cuidados pero las invisibilizamos dice

hago mía sus palabras que no dejen de hacer estos trabajos para que seamos conscientes de lo que suponen no dejemos de trabajar en este parlamento para que se visualice esta problemática desde euskal herria bildu no dejaremos de hacerlo

dijo en mil novecientos treinta y siete nunca hay dinero suficiente para la vida pero siempre se encuentran dinero para armamento nuclear y convencional

no es un tema nuevo y la verdad es que ojala no hubiera tenido que venir una iniciativa como esta a esta cámara una vez más

no hubiera hecho falta pero la verdad es que es un tema es un tema es un tema

que no solo no se acaba de resolver sino que en nuestra opinión al menos pues parece que no se avanza en positivo etxeko langileen lan baldintzak

sobre la mesa política esta cuestión hace tiempo que está y hace tiempo también en anteriores legislaturas ha habido testimonios de personas mujeres fundamentalmente trabajadoras de este sector

especiales y sí tal vez de especial dificultad para resolverlos pero por lo tanto pues especial motivo para que también hagamos desde las instituciones especiales esfuerzos para abordarlos y resolverlos nosotros por eso también hemos hecho diferentes iniciativas a este respecto porque la verdad es que como ya hemos comentado alguna vez la situación de las trabajadoras del hogar

lamentable y necesitan ya algún tipo de avance que les pueda vislumbrar o hacer ver que hay esperanza porque yo creo que

pues puedo entender perfectamente la frustración que pueden sentir cuando una y otra vez reclaman lo que están pasando

en que seamos capaces desde las administraciones públicas en hacer cumplir la ley porque eso pasa los derechos laborales de las trabajadoras del hogar

como en otros muchos sectores y la ley no se cumple de manera

que en otros sectores por eso pues nosotros teníamos una amplia coincidencia con la iniciativa que presentaba eh bildu

entre diferentes grupos que a nosotros nos parece

tiene que ser un último toque de atención a este gobierno para que haga

aunque luego podremos debatir o discutir sobre otras cuestiones que afectan a este colectivo que tal vez desde nuestras competencias autonómicas no podamos hacer pero hay cuestiones que sí se pueden hacer y que en nuestra opinión no se están abordando con la suficiente

en la iniciativa se aborda la cuestión una cuestión que es importante y que creo que de alguna manera sí que podemos avanzar en ella desde nuestras competencias

la detección de los accidentes laborales sabemos las limitaciones legales que puede tener por ejemplo inspección de trabajo en este sentido también

osalan en este sentido pero precisamente por eso nosotros pensamos que tanto inspección de trabajo como osalan pues deberán hacer con este sector concreto un especial esfuerzo y abordar una especial estrategia para esta cuestión se incluye en la transacción

instar a que se traiga la guía de prevención que ha comentado la señora etxebarrieta

nosotros proponíamos tres meses se propone en el cuarto trimestre si no recuerdo mal bien no vamos a pelear por las fechas cuando lo que se propone es traerlo este año pero esta guía viene ya

mucho antes y ya se ha dicho también pero creo que hay que recordarlo por la importancia que tiene porque el departamento ya elaboró una guía y fue como se mencionó en la comparecencia una auténtica chapuza no solo estaba mal elaborada

que estaba elaborada sin conocimiento real de la realidad del sector de trabajadoras del hogar sino que además tenía errores jurídicos o errores de conceptos legislativos en la propia guía

el departamento era consciente al menos de que no era una buena guía hasta el punto de que no tenía ningún tipo de difusión la guía y

y mejor porque viendo luego cómo nos contaron de chapuza que era la guía pues la verdad es que mejor

ya había tenido tiempo ya había tiempo de sobra para que se hubiera elaborado esa guía pero no obstante pues para el cuarto

suponemos que estará sin falta y el diagnóstico el diagnóstico también viene muy tarde el diagnóstico este pleno aprobó que se hiciera en nueve meses que yo creo que es un periodo

para elaborarlo y los nueve meses si no recuerdo mal caducaron en diciembre dos mil diecisiete estamos en junio de dos mil dieciocho parece que va a llegar

no ha llegado es verdad que la consejera de trabajo ha explicado que han encontrado especiales dificultades a la hora de poder elaborarlo ha explicado que quieren elaborarlo bien ha explicado las decisiones que han tomado y la metodología que decidieron para elaborarlo bien y que por eso se retrasa y esas explicaciones bien las han dado pero lo cierto es que

bueno nosotros podemos ser pacientes y si ahora aprobamos también con los grupos que apoyan al gobierno

pues también estamos dispuestos a esperar pero como decía antes creo que este tiene que ser ya

cuestión si no queremos generar más frustración en las trabajadoras de este ramo nosotros proponíamos en nuestra enmienda que se elaborara un plan de acción lógicamente un plan de acción

una vez conocido ese diagnóstico pero que se tiene que elaborar difícilmente del diagnóstico se va a concluir que no hace falta elaborar un plan de acción cuando todas y todos sabemos la situación lamentable en la que trabajan este colectivo fundamentalmente de mujeres por lo tanto proponíamos y así se ha incluido

tiene que tener dos objetivos concretos mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras de hogar y también que parece una obviedad

es decir las trabajadoras de hogar en este momento están en unas condiciones de trabajo que no solo son malas sino que en muchos casos ni siquiera se respeta

y por lo tanto una administración pública tiene la obligación de hacer cumplir esa legalidad muchas veces oímos en esta cámara esa frase de que la ley hay que cumplirla y la ley hay que respetarla pues nosotros creemos que la administración pública está obligada en un tema como este a hacer especial hincapié y a conseguir que efectivamente la ley se cumpla y que por lo menos las condiciones de trabajo recogidas en la ley

que sean respetadas también se incluye finalmente la cuestión

pensamos que el hecho de que lanbide sea el referente a la hora de establecer

y empleadas puede traer dos cosas buenas en primer lugar evitar abusos que se dan por parte de agencias de colocación en estos momentos abusos importantes

estamos seguros de que eso garantizaría un mejor y mayor conocimiento tanto de deberes y derechos que tienen las trabajadoras del sector y quienes deciden emplear a una persona trabajadora de hogar

pensamos que vienen tarde varias de las cuestiones

que como ha dicho la señora etxebarrieta muchas de ellas ya se habían aprobado en este parlamento en diferentes ocasiones y no se han ejecutado y por lo tanto pensamos que este tiene que ser y así se lo pedimos también al gobierno que está escuchando

sector tan especial y que está en estas condiciones tan lamentables eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

sí gracias presidenta hoy debatimos sobre las condiciones y derechos laborales de las empleadas de hogar ya se ha dicho que no es la primera ocasión que debatimos en este parlamento en esta materia en concreto también lo debatimos con la iniciativa

y el treinta de mayo del año pasado también se debatió en la anterior legislatura y en base a un mandato parlamentario del dos mil once se hizo

en la comunidad autónoma vasca que es el último estudio realizado en la intervención que realicé en febrero del año pasado hacía referencia cómo había ido cambiando la legislación referente a las empleadas de hogar a lo largo de estos últimos años

de la misma en el dos mil once y que inició los pasos de la equiparación de los derechos

con los trabajadores del régimen general de la seguridad social y hablamos también aquel momento de la importancia de ratificar el convenio ciento ochenta y nueve

en los mismos se reconoce el trabajo doméstico como cualquier otro trabajo que garantiza que los trabajadores y trabajadoras del hogar sean tratados en igualdad de condiciones

firmamos con el apoyo del grupo nacionalista de socialistas vascos eh bildu y elkarrekin podemos se instaba al gobierno del estado para que procediera

en este punto la enmienda transaccional pero se aprobó con el apoyo del resto de los grupos políticos de la cámara entonces decíamos que habían pasado seis años

ya son siete los que llevamos de retraso sin que ese convenio se ratifique por otra parte y dado que el último estudio referente a las condiciones de trabajo de la empleadas de hogar era del año dos mil once

se instaba al gobierno vasco para que se realizara un informe diagnóstico de las situaciones de las trabajadoras en la comunidad autónoma vasca y se daba un plazo de nueve meses

se elaborara un estudio que definiera con una mayor claridad la dimensión del problema recopilara los pasos que hasta la fecha se han dado por los diferentes instituciones y plantee medidas a aplicar a este estudio no se le marcaba en

aquella transaccional ningún plazo tal como manifestó la consejera de trabajo y justicia

de mayo aunque en primer punto se instaba al gobierno en general y el tercer punto se llegó al acuerdo de que dentro del gobierno de que ambos se realizaran desde el instituto vasco de seguridad y salud laborales desde osalan inmediatamente se pusieron en marcha lo que pasa es que

que tenía una gran complejidad que suponía concretar y definir todos los colectivos de las personas trabajadoras del hogar para aprovechar al máximo esa oportunidad

se vio que dentro de osalan la información que tenían era más limitada y se consideró que podía ser mucho más positivo que si hiciera desde el departamento de sociología y trabajo social de la facultad de ciencias de comunicación de la upv

que se quería que se siguiera y el alcance de esta y además dentro de esa metodología se le pidió

que tuviera participación abierta al sector de grupos representativos de las trabajadoras de hogar y

del instituto nacional de estadística del eustat y diversos estudios sobre la materia

de este trabajo vamos a obtener los informes el diagnóstico y las medidas

que tenemos que tomar pero por otro lado se añade el once de mayo algo que en un principio no estaba metido se le mete dentro de esos estudios

un nuevo punto entonces se le encarga también que se valoren los efectos que tendría la suspensión de los artículos catorce punto tres del decreto ciento setenta y siete barra dos mil diez del veintinueve de junio

treinta y uno barra dos mil diecisiete de marzo del dos mil quince respecto de derechos de trabajadores del hogar acceder a las prestaciones

y adoptó las medidas oportunas derivadas de los resultados de dicho análisis por tanto

inicialmente solicitado en febrero se amplía en dicha fecha y se pone también ese estudio en marcha junto con el otro estudio también que se había solicitado que se había puesto ya en marcha anteriormente a este

dijo la consejera el otro día partida presupuestaria para ello y se incluye dentro de los presupuestos del año

la realización de los una vez dado estos pasos en la actualidad

bastante avanzados en cuanto sean concluidos se remitirán a este parlamento por otro lado hacía referencia a la guía de seguridad y salud laboral ya está concluida en estos momentos lo que falta es la edición y la traducción de esa guía al euskera por tanto evidentemente

en breve y eso se ha hecho sin necesidad de que se estableciera o se exigiera entonces esa

por parte del grupo elkarrekin podemos por parte del señor hernández ponía usted de manifiesto que hay que hacer las cosas hay que cumplir los plazos

anteriormente no tenía ningún plazo no tenía ninguna exigencia pero como la anterior guía se había hecho

y no era bueno el resultado pues las cosas evidentemente hay que hacerlas bien

estaba incompleta inconcreta no estaba muy completa y era mucho mejor

hacer una nueva pues es lo que se está haciendo ahora mismo por parte del departamento de trabajo

que se ha marcado sin ningún tipo de problema por eso nosotros

estamos muy satisfechos de la enmienda transaccional que hemos firmado yo creo que aunque dentro de esta enmienda se ponen plazos

el diagnóstico el estudio dentro del último cuatrimestre de este año desde luego probablemente todo va a estar aquí se van a cumplir

el porqué y las dificultades que se han tenido para poder cumplir el primer plazo que se daba para uno de los casos

febrero del año pasado por otro lado se incluyen otros puntos novedosos y nuevos como el que se revisen los protocolos de osakidetza de atención de identificación de accidentes desde osalan

también somos conscientes de que evidentemente eso supone una mejora porque cuando se produce un accidente de trabajo y hay una comunicación del accidente de trabajo ese accidente se registra en el cómputo oficial

se pueden detectar accidentes que no se han considerado en un primer momento como tales y poder recuperar ahí

no se hubiera tenido comunicación de la realización del mismo yo creo que eso también es positivo y además se meten otros puntos

es positivo y también la referencia a que si del estudio

que hacer una revisión de las campañas de la inspección de trabajo que ya están en marcha desde hace tiempo pero que se necesite revisarlas para mejorarlas

se haga que se ve que de los datos no hace falta tener que hacer ninguna revisión porque vale con lo que se está haciendo pero no se hace no se hace y ya está pero si se ve que efectivamente aportan

y se realiza que yo creo que eso es positivo para el sector en todo caso desde luego yo agradecer todo el esfuerzo realizado por los grupos hoy para llegar a esta transacción mi grupo también está de acuerdo en que esta transacción es buena y estoy convencida
de que los plazos se cumplirán nada más y muchas gracias eskerrik asko sanchez andrea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

realidad que creo que todos compartimos realmente la respuesta fue insuficiente porque hoy me quería centrar en esta cuestión

falta de determinación por eso me gustaría volver a la interpelación volver al día de la interpelación usted pedía explicaciones a la consejera sobre tres cuestiones tres cuestiones una explicación sobre la guía de la seguridad y salud en los trabajos del hogar

los dos estudios ambos contenidos en sendas proposiciones que ya se han comentado no de ley aprobadas en este parlamento una en febrero del diecisiete que planteaba la necesidad de un diagnóstico de situación de las personas trabajadoras del hogar y también del

conocer los pasos dados y las medidas que se planteaban a futuro y otra de mayo

planteaba la valoración de los efectos de la suspensión de un par de artículos de dos decretos que también se han comentado sobre accesos a prestaciones

del empleo del hogar y de las agencias de colocación desde la inspección de trabajo lo que es objetivo es que la consejera respondió yo he revisado esas actas y la consejera objetivamente responde a las tres cuestiones responde a las tres cuestiones usted considera subjetivamente

y así lo dice en la justificación de la moción dio respuesta insuficiente es objetivo creo sin ninguna duda que contestó y las diferencias en el cómo es las diferencias que nos pueden separar a usted y a mí para usted

notable usted y yo subjetivamente no coincidimos está claro en esta cuestión y yo yo desde mi humilde posición creo que puedo defender mi subjetividad sinceramente

si la consejera hubiese terminado su respuesta después de haber expresado con rotundidad el compromiso del gobierno que así lo hizo señor hernández

expresado ese compromiso con la situación de las personas trabajadoras y la constatación de que es un asunto complejo

lograr lo que usted propone pero también lo que los demás proponíamos en su día yo le reconocería a usted señora etxebarrieta que la consejera

pero realmente no fue así realmente no fue así por eso yo considero que la respuesta no es insuficiente después de expresar esa preocupación y constatar la complejidad que creo que todos llegamos a entender y los que

esta cuestión llegamos un poco más allá de entenderlo de hecho

vivas en este sentido realmente porque entendemos que esta cuestión es compleja

no se paró ahí la consejera la consejera pasó a analizar detalladamente la situación teniendo en cuenta las diferentes ópticas laboral legal de siniestralidad y nos puso al día de lo que ya se estaba haciendo en aquel momento de lo que en aquel momento ya estaban llevando a cabo

la guía en primer lugar la guía para la seguridad y salud de los trabajos del hogar antes de la comparecencia nos decía la consejera de los representantes de la asociación de trabajadoras del hogar ya estaban detectados

y ya se estaba trabajando en su modificación modificaciones tales como las nuevas fichas de golpes atrapamientos iluminación temperatura

se han revisado o se habían revisado la totalidad de las recomendaciones preventivas se incorporan

y además se recoge un glosario de términos para una mejor comprensión

llegue a ser comprendida y nos anuncia además en cuanto a esto y nos dice en breve la tendremos la segunda cuestión los estudios derivados de los acuerdos parlamentarios sabemos y ya se ha comentado que en el momento de aprobarse el acuerdo de febrero osalan se puso rápidamente a trabajar en un inicio con recursos humanos propios después de una primera fase que se constató que para elaborar un buen estudio que pudiera cumplir con el mandato

había que utilizar otros recursos por ello se contacta con el departamento de sociología y trabajo social de la facultad de ciencias sociales y de la comunicación de la upv

indican la determinación de la metodología el objetivo el plan de trabajo

como también ha comentado la señora sánchez estando en elaboraciones ese primer estudio aquí les instamos a realizar otro estudio

es claro que el primer estudio tiene un enfoque esencialmente sociológico también nos lo recordaba la consejera sin embargo el segundo estudio tiene un enfoque prácticamente o casi exclusivamente

son dos estudios diferentes en cualquier caso me gustaría subrayar el compromiso del gobierno con esta acción con los estudios acción

dotación presupuestaria que también se ha comentado y anuncio de la consejera de estar a punto de finalizarse y ser entregados a esta cámara en señal de respeto a nuestros acuerdos en tercer lugar el control el control de la inspección de trabajo saben y ya se ha explicado el control que realiza la inspección a pesar de que todos conocemos la dificultad con que se hace esta cuestión es una dificultad de la que no podemos huir es muy difícil acceder a los domicilios particulares

tres cuestiones tres explicaciones solicitadas pero también tres respuestas detalladas también tres respuestas concretas y de calidad en cualquier caso también efectivamente nosotros firmamos el acuerdo nos parece un buen acuerdo entendemos que ya

como nos decía la consejera pero en cualquier caso firmamos el acuerdo porque nos parece interesante no tanto por lo que

recordar que llegue sino por alguna otra cuestión fundamentalmente el recogido en el punto cuatro

después de los diagnósticos sí me gustaría también comentar del acuerdo el último párrafo

el texto al que hemos llegado en ese último punto relacionado con lanbide mejora sustancialmente el planteamiento inicial y

del mercado ajusta este punto digo a las funciones de lanbide sin más agradecerle señora etxebarrieta

aportar en el acuerdo y al resto de grupos también agradecerles su apuesta por el acuerdo eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta buenas tardes a todos igual alguna de las cuestiones que voy a plantear no me corresponde a mí igual le correspondía más

cualquiera que hubiera oído hoy su intervención aparte de la defensa numantina del gobierno y del departamento

lo ha defendido infinitamente mejor que usted pero aparte de esa defensa numantina

y que uno presenta una interpelación y si hay una contestación por parte de la consejera

a todo de verdad o sea yo creo que a estas alturas

pero la cuestión además claro que contestó otra cosa es que contestase satisfactoriamente alguna de las cuestiones y otra cosa es que los compromisos que pudo haber compromisos

pensase que los compromisos podían ir mucho más allá es verdad que con relación a este colectivo ha habido numerosas iniciativas y la señora sánchez no ha podido sustraerse de una iniciativa que

en la que uno de los puntos o los otros este grupo votó a favor con uno de los puntos

que ya podemos estar todos tranquilos que va a solucionar absolutamente todo con lo cual el punto en el que nosotros nos abstuvimos ya vamos

todo todo solucionado porque el señor sánchez ha llegado aquí

no tendremos que instar al gobierno de españa nunca más pero bien a lo que vamos

no superior a nueve meses que se diagnosticase la situación que sufrían las mujeres trabajadoras

teniendo en cuenta en el estudio tanto la parte empleadora como la parte trabajadora y vaya desde aquí

de este colectivo que es verdad que en ocasiones está invisibilizado pero en el que yo la primera sin la aportación y el trabajo que realiza este colectivo en muchas ocasiones el trabajo que realizamos mujeres no lo podríamos realizar o desde luego sería

difícil y es verdad que luego se solicitaba otro estudio distinto a través de osalan para definir

todos los pasos dados hasta ahora y por las diferentes instituciones planteando medidas a aplicar el gobierno vasco tenía hasta noviembre lo he contado

y no se cumplió y ha pasado ya mucho tiempo y seguimos sin el diagnóstico

que yo no entiendo yo creo que cuando se plantea este estudio y normalmente cuando uno plantea las iniciativas el gobierno es el que dice a los grupos que apoyan al gobierno si pueden aceptar si no cómo se hace hombre no fueron capaces en ese momento

el departamento de sociología y trabajo social de la facultad de ciencias sociales y de comunicación de la universidad del país vasco es el que va a encargar el estudio qué pasa que mientras tanto vamos ganando tiempo no un estudio que hace tiempo que ya tenía que haber estado acabado

a sus propias posibilidades con el trabajo que tiene ahora

y como digo se va ganando tiempo nosotros consideramos que ese diagnóstico es importante que es importante tenerlo cuanto antes que se remita a esta cámara y como se ha dicho aquí para que se puedan anunciar dichas

mejorar su situación porque es verdad que las trabajadoras en este momento no tienen acceso a esas ayudas económicas del gobierno vasco durante las excedencias y reducciones de la jornada por cuidado es verdad que yo en ese momento apoyé una enmienda y firmé una enmienda de transacción con los grupos que apoyan al gobierno

no porque no considerase que era necesario acabar con esta discriminación sino porque se decía que para acabar con esta discriminación había que estudiar si con la eliminación de los artículos del decreto era suficiente o había que ir más allá o había que hacer otro tipo

a expertos en derecho yo en el punto anterior puedo tener mis dudas y no se puede hacer con el personal del departamento

de un artículo en un decreto no existen en el gobierno vasco expertos jurídicos que puedan hacerlo

yo con todo el funcionariado que tenemos en el gobierno vasco con los expertos en derecho que tenemos en el gobierno vasco que tengamos que encargar fuera

cómo derogar un artículo los efectos de de un artículo o cómo esa discriminación que ahora tienen las trabajadoras del hogar puede darse fin yo me quedo perpleja

pero bueno si tienen que ser expertos externos en derecho los que tengan que realizarlo

no daba para tanto pero bueno y

partida presupuestaria antes pues entonces y que había que contratar con empresas externas en este presupuesto de dos mil dieciocho se había habilitado

nos parecen correctos que lleguen porque ya digo el primero de los estudios es más complicado pero el segundo la verdad

tan difícil pero bueno que llegue y que llegue cuanto antes también

como se ha dicho se ha pedido en esta cámara la intervención de la inspección de trabajo no tanto en las condiciones que tienen las trabajadoras que también en los propios hogares sino también la inspección de las agencias de colocación que eso no es tan complicado o sea es decir yo puedo entender que es complicado el acceso al hogar y el ver

de colocación nosotros no lo vemos tan complicado se vuelve a pedir en la moción y nosotros

consideramos que es bueno que es positivo que se realice

que se ha modificado que yo he de decir que estaba absolutamente de acuerdo con la redacción original pero bueno como la iniciativa y se ha llegado a un consenso yo estaba absolutamente de acuerdo con la redacción original es verdad que lanbide

por el propio viceconsejero que para buscar empleo a lanbide no vayas yo hasta ahí lo puedo aceptar pero en cualquier caso tampoco

que cruzar de brazos y creemos que en cualquier caso tenemos que intentar

que realmente sea quien ponga en conexión a las demandantes de empleo en este caso porque son sobre todo mujeres y a los y las empleadoras y creo que si

porque evidentemente tienen una vulnerabilidad mayor y creo que este colectivo que esa intermediación se pudiera hacer a través de lanbide

a mí me parece absolutamente lógico a mí me parece absolutamente lógico

en este caso que dependen de las agencias de colocación yo desde luego si tengo que contratar a una persona

que si la contrato a través de una agencia de colocación porque sé perfectamente que si no la contrato yo directamente si la contrato por unas

lanbide va a ser mucho más cuidadoso en el cumplimiento de los procedimientos legales que una agencia de colocación entonces en ese sentido que sea un objetivo prioritario que se utilice a lanbide

no lo entiendo que no se vea bien a mí me parecía absolutamente positivo pero bueno en cualquier caso apoyaré la enmienda a la que se ha

permíteme señora presidenta que tardo muy poquito en la comparecencia de las representantes de la asociación de las trabajadoras del hogar la verdad es que esta parlamentaria

ni había tenido conocimiento pero se quedó perpleja de algunas de las cuestiones que allí se dijeron voy a utilizar las palabras porque me parecen absolutamente fundamentales

a las trabajadoras interesadas y al mandato parlamentario

no se ha divulgado de ninguna manera ni siquiera está colgado junto con el resto de guías en la página osalan

no es de extraño que la guía esté escondida porque ni es útil

ninguna formación y para rellenar folios hay una segunda parte en la que se resume la legislación

del empleo de esas trabajadoras la señora consejera señalaba en su contestación de que antes que se sustanciara esta comparecencia ya se habían detectado por parte de los responsables de osalan elementos de mejora hombre yo creo que decir que había elementos de mejora en la guía es utilizar un eufemismo

amable amable y generoso porque lo que había era muchísimos

porque de verdad que dejaba perpleja y perplejo a cualquiera

es necesario dicen que se está haciendo ya realizar una nueva guía una guía que es importante para las propias trabajadoras y yo lo comentaba con la proponente hoy pero también para los empleadores y luego es verdad con relación a la metodología de la recogida de datos de osalan pues que

osalan recoge el número de accidentes laborales y que recoge

es más complicado que podrían dar pero en cualquier caso y yo en eso sí estaba de acuerdo con la proponente lo que se debiera

y que existen datos que por suceder en el ámbito

es adecuado para ver que los datos no son completos porque si no al final

insuficiente por supuesto que insuficiente porque nos decía en breve lo tendremos por si acaso nosotros volvimos a preguntar con preguntas por escrito no se nos respondió la pregunta era cuándo iba a estar no se nos respondió cuándo iba a estar y

en el acuerdo al que hemos llegado las fechas las habéis puesto vosotras nosotras no habíamos puesto ningún tipo de fechas zuek jarri diozue

guk jartzen genuen ahal bezain arinen heltzea por supuesto que insuficiente parece que para vosotras también porque os pareció importante meter el asunto de la fecha

insuficiente por supuesto que trabajo insuficiente no es solo el trabajo de esta consejera viene de largo por supuesto pero seguiremos insistiendo para eso estamos

en una anterior comparecencia si no apaga y vámonos

lo habíamos decidido si ya en algún momento se llega a un acuerdo para qué seguimos pues para qué estamos aquí no sé son las diecisiete cero un jueves

igual estaría mejor no sé sinceramente eta puntu horietan sartu ez izana gaur egindako interpelazioa

zure hitzartze guztia harrituta utzi nau eskubide osoa daukazu nik eskubide osoa daukadan bezala esateko que me pareció insuficiente y que por eso metí a una moción en los dos años que llevo aquí también yo

respuesta insuficiente aquí va moción es la que he visto repetida pero muchísimas veces si me enseña una fórmula mejor

a eso había venido a enseñarme cómo tenía que hacer las mociones

si me dice una fórmula mejor la próxima vez la meto porque seguiré haciendo preguntas y me seguirán pareciendo insuficientes pero

pondré que no fueron las que nosotras esperábamos queríamos un poco más de concreción

plazos porque ya se ha preguntado varias veces por escrito oral y varias respuestas han sido ya en diferentes ocasiones que en breve

creo que tampoco ha habido mucha discusión cuando hemos aceptado

plazos poníamos tres meses pensábamos que para septiembre esto ya podía estar

entre otras cosas porque uno la guía nosotros pensamos que sí que podía estar ya elaborada que podía haber estado ya elaborada porque la guía

hay que mejorarla yo espero que no la mejoren yo espero que lo que nos presenten sea una guía nueva

chapuza y por lo tanto nosotros pensamos que la guía

ya podía haber estado porque estamos de acuerdo que hay que hacerla bien

sobre todo después de ver la que se hizo pero es una guía no es la enciclopedia entonces yo creo que cuando pasaron por la comisión ya hace unos cuantos meses entonces me parece que esa cuestión ya podía estar entonces creo que cuando nosotros ponemos se habla de un plazo que es a final de año pues reprocharnos de alguna manera que se hable de plazos

un poco excesivo y en cuanto al diagnóstico yo ya he dicho en mi anterior intervención que habíamos escuchado el argumento de la consejera y no ha puesto ninguna pega ya nos han explicado

abordar de qué manera precisamente para hacerlo bien vale ninguna pega cuando llegue esperemos que esté bien hecha pero

del informe jurídico para la otra cuestión para ver cómo afectaría la eliminación de los puntos del decreto que impiden que las trabajadoras de hogar puedan acceder a las ayudas a la conciliación bueno pues ya se ha dicho aquí también es un informe jurídico

nos parece a nosotros que le añada una dificultad excesiva a ese diagnóstico para alargar tanto los plazos en cualquier caso pues seguro que cuando traigan el diagnóstico será un gran diagnóstico

vamos a verlo hay una cuestión que a nosotros nos parece importante

en la transacción una cosa que traíamos nosotros en nuestra enmienda que es la del plan de acción que a nosotros nos parece que es muy importante pero luego

finalmente se ha recogido una fórmula que a nosotros nos parece insuficiente porque viene a decir que una vez que esté también el diagnóstico vamos a ver si es necesario reformular

si precisamente reconocemos que inspección de trabajo tiene especiales dificultades para abordar la inspección sobre el trabajo en las trabajadoras de hogar porque son trabajadoras pues a nosotros nos parece que está más que claro que inspección de trabajo

no basta con que nos limitemos a decir que hay dificultades lo he dicho también en mi primera intervención precisamente si este sector tiene unas dificultades especiales para inspección de trabajo y para osalan

pues precisamente por eso el gobierno tiene que dar un impulso para que se haga un especial esfuerzo y a nosotros nos parece que se podía haber recogido

en que hay que replantearse cómo inspección de trabajo podría abordar la inspección sobre el trabajo de las trabajadoras de hogar

y luego se nos dice por parte del señor aiartza que el gobierno vasco ya ha expresado con rotundidad su compromiso con las trabajadoras de hogar bueno yo no he dicho nada

es que este sector está en muy malas condiciones

durante mucho tiempo por lo tanto junto a la rotundidad en el compromiso pensamos que hay que demostrarla en los hechos y creemos que la iniciativa que finalmente aprobamos hoy pues sí

que sobre algunas cuestiones que vienen replanteándose en diferentes ocasiones pues ya debería ser un último toque de atención para que el gobierno

a ver señora llanos la veo un poco picada la he visto un poco picada en su primera intervención yo encantada el que le haya gustado mucho más la intervención del señor

yo no sé si es que le ha sentado mal que que ha pasado otro año más sin ratificar el convenio ciento ochenta y nueve de la oit y se me ha mosqueado o se me ha mosqueado por otras cosas que vienen últimamente ocurriendo no sé porque

lo que es una realidad es que ha pasado un año más sin que ese convenio haya sido ratificado pero no se preocupe que ya no se lo volveré a pedir a usted

de la oit por otro lado por parte del departamento de trabajo y justicia y por parte de osalan

se consideraba que era mucho más completo el resultado si se encargaba a la universidad

más cosas se ha considerado así mejor precisamente para conseguir un mejor resultado trabajo que se está realizando y así se ha hecho entonces aquí se ha dicho hay que hacerlo rápido pero si se hace rápido y luego no gusta el resultado como ocurrió al final de la anterior legislatura con la guía de prevención de riesgos laborales pues luego ha salido algo que no nos gusta nada porque se hizo mal y rápido y tal las cosas hay que hacerlas bien y es lo que se está haciendo se ha visto que

con a conciencia para que salga lo mejor posible y sea útil para las trabajadoras y los empleadores

y además se apuesto un plazo muy amplio de acuerdo que usted ha puesto tres meses y probablemente estará para septiembre porque ya hemos indicado que la guía está terminada que está pendiente solamente de edición y traducción con lo cual

pues de aquí a poco pues eso me imagino que se podrá

pero desde luego estoy convencida de que va de que probablemente sobrará hasta plazo y además el diagnóstico y el estudio realizado pues ya están también bastante avanzados y probablemente también pues podrán estar concluidos antes de que finalice ese y se está buscando hacer de una forma más completa posible precisamente para tener ese estudio de una forma mucho más completa y mucho más amplia de lo que se ha hecho

anteriormente en este tema luego respecto del tema de los accidentes de trabajo señora llanos usted

que porque no decíamos que no se recogían todos

oficialmente en el cómputo oficial llegan

de los trabajadores dados de alta en el sector de empleadas de hogar precisamente no te va a llegar

de trabajo de una trabajadora o de un trabajador que no esté dado de alta con lo cual

que se ha producido ese accidente de trabajo pasaría a formar parte de ese cómputo oficial pero obviamente

la realidad de la totalidad de los accidentes de trabajo que se producen como pasa también con respecto de trabajadores que puede pasar en el régimen general que un trabajador que no esté dado alta precisamente ese accidente de trabajo no se va a comunicar oficialmente porque automáticamente

de alta se van a cumplir los plazos y la guía como he señalado

señor hernández desde luego y se está realizando de la forma más completa

que nos tenemos que quedar con el esfuerzo realizado por todos con que este trabajo se

en breve de una forma pues que sea lo mejor posible y mejore y eso sirva para mejorar las condiciones de las personas trabajadores del hogar trabajadoras del hogar y

también pueda servir para información para sus empleadores nada más y muchas gracias

creeré que aquí perdemos el tiempo me parece tremendamente interesante y productivo lo que aquí hacemos

para qué estamos decía pues para qué estamos pues sin pretender darle ninguna clase de esto porque a ver si luego yo creo que

para impulsar la acción de gobierno y esto es una acción de impulso de la acción de gobierno también mezclada con un poco de control y me parece estupendo

sin embargo yo puedo entender que a mi juicio el gobierno ya vaya a un gran ritmo son diferentes percepciones con lo cual insuficiente por cierto que es término suyo no es término mío yo solo digo que usted lo califica

la insuficiencia y la suficiencia señora llanos lo que a usted es insuficiente y usted lo califica así yo digo

procurado en cualquier caso demostrar o intentar demostrar es que

dificultades de la complejidad de la cuestión se está haciendo y se está haciendo y se está haciendo a buen ritmo y las cosas se están haciendo

ese día y yo defiendo esa posición sin más

señora llanos le ha costado llegar decía usted al punto en concreto ya le ha costado pero minuto y medio después de terminar ya su tiempo

a ese punto que quería llegar que es autocomplacencia

yo creo que no es autocomplacencia pero lo que le decía a la señora etxebarrieta es una percepción ese efecto que nos contaba entre interpelación y moción

y que se utilice me parece un ejercicio lógico ese incluso automatismo en muchos casos

bueno pues nuestro grupo parlamentario en madrid tiene que ser muy selectivo porque no tiene capacidad de registrar tantas interpelaciones con lo cual

tantas mociones pueden presentar muy pocas ustedes aquí sí que presentan

cadena de montaje vamos que nos podrían dar a nosotros un máster sobre esta cuestión sin más

en el punto concreto reconoce que la consejera respondió a todo a todo y a usted le puede parecer sí sí usted ha reconocido que la consejera respondió a todo pero decía de forma insuficiente volvemos a la anterior cuestión

más que la suficiencia de esa respuesta y de hecho se va a demostrar en breve y más allá de eso sigo pensando y sigo valorando

el señor hernández nos ha recordado ahora mismo algunas de ellas eskerrik asko eskerrik asko

lo del automatismo interpelación moción mire concretamente yo he presentado algunas interpelaciones en esta cámara que luego no han sido seguidas de moción

pero en cuestión de percepciones pues qué quiere que le diga si ustedes en las percepciones son expertos la diferente percepción cuando se está en el gobierno o cuando se está en la oposición dice que el gobierno va a buen ritmo

va a un buen ritmo porque ustedes ahora apoyan el gobierno sabe lo que le pasa señor aiartza que cuando ustedes estaban en la oposición en el gobierno de patxi lópez

consideraban que era ir despacio y ahora que están en el gobierno

le parece una velocidad ultrasónica eso son las diferencias

en las percepciones y dice que yo he dicho que respondió a todo yo he dicho que contestó contestar y responder son dos cosas diferentes

que es dar cumplida cuenta de las cosas que se le pedían yo creo que eso ya es otra cosa diferente

yo enfadada en absoluto yo lo que le digo es que es verdad que es un departamento

lo dejo ahí y con relación a lo de la oit señora sánchez

en el que el gobierno del partido popular se abstuvo en esa iniciativa porque en todos los demás puntos votó a favor

los problemas de españa están solucionados pero vamos de qué manera entonces ya ahora se va a ratificar ya inmediatamente o no

porque ustedes son expertos se lo he dicho en algunas ocasiones y en esta cámara tenemos prueba de ello

no no traigo aquí porque no me da tiempo intervenciones del señor itxaso que son míticas y que ahora ustedes con patatas ustedes se lo he dicho en muchas ocasiones

pero vamos pero es que de la pancarta al gobierno también tienen una facilidad enorme con lo cual eso de donde dije digo digo diego y

y damos más tiempo y ya y si acaso creo una comisión y encargo un estudio y lo saco fuera vamos que de eso saben un rato largo yo en el gobierno de españa no sé pero en el congreso de los diputados porque no he estado pero en esta cámara he visto ejemplos pero vamos

para aprender y yo se lo he dicho con los plazos el primer

me parece más complicado pero de verdad para ver los efectos de la derogación de un artículo

consultar a expertos en derecho que no estamos reformando la constitución señora sánchez

pero de verdad que con ustedes la redacción de la constitución desde el setenta y ocho todavía no teníamos porque vamos y para eso hace falta tanto plazo y no solamente eso no se puede hacer por los propios funcionarios jurídicos que tiene el gobierno vasco y hay que encargárselo a expertos en derecho

yo creo que es para hacérselo mirar y termino con los accidentes de trabajo yo lo que le decía señora sánchez con relación a este tema es que los accidentes de trabajo en una empresa claro que se computan todos

es público es notorio hay publicidad y se computan todos en un domicilio se computan aquellos de los que se dan cuenta

que no se dan cuenta por múltiples razones por múltiples razones pero no se dan cuenta con lo cual

dentro del hogar no es completa y lo que se solicitaba era exclusivamente eso decir que los datos que existen no son datos completos era tan sencillo como eso reconociendo la complicación que está en recoger todos esos datos y la hemos reconocido

y que hay más accidentes laborales entre las empleadas del hogar que las que están en las estadísticas por qué porque si no caemos como casi todo en este gobierno en la autocomplacencia y eso

hoy traemos a esta cámara una proposición no de ley relativa

a más estimaciones de desempleo involuntario desempleo involuntario que y desgraciadamente está más presente que nunca desde elkarrekin podemos tenemos claro y así lo hemos expresado en las negociaciones que hemos estado

en el ojo de nadie ni del gobierno ni de los partidos que lo sustentaban el objetivo de la iniciativa

que poco o nada tiene que ver con aquella de mil novecientos sesenta y cuatro cuando se realizó la primera encuesta de población activa una realidad en la que el desempleo

como se medía en el siglo veinte porque vivimos en el siglo veintiuno y como tal debemos dar respuesta a los problemas con métodos del siglo veintiuno no del siglo veinte actualmente sabemos que

sabemos que existe el desempleo involuntario sabemos que existe la parcialidad involuntaria y sabemos que existe la temporalidad involuntaria

y la realidad presente es totalmente distinta a la del siglo pasado porque ha cambiado coexistimos

bauman definió y nadie en esta cámara puede negar que la tasa de desempleo se basa en una definición

de lo que implica no tener un empleo decente una definición limitada a los factores y a los aspectos del siglo veinte de acuerdo con la definición del desempleo

si están sin trabajo disponibles para comenzar a trabajar dentro de dos semanas y buscando activamente empleo en el momento que se realice la encuesta

señaló que existen definiciones más amplias que están siendo relevantes para evaluar el grado general de holgura en los mercados de trabajo de los nuevos tiempos añade además el banco central europeo que dos grupos son particularmente relevantes de consideración primero

que están sin trabajo pero que no cumplen los estrictos criterios de disponibilidad de trabajar

y en segundo lugar aquellas personas que trabajan a tiempo parcial pero quieren trabajar más horas o quieren trabajar a tiempo completo el primer grupo cae dentro de la categoría

cae dentro de la categoría de empleada si alzamos la vista y miramos un poco a europa donde por ejemplo eurostat estudia estas cuestiones

sugiere que el desempleo mirado de una forma más amplia afecta actualmente al dieciocho por ciento de la fuerza de trabajo de la zona euro

es casi el doble del nivel medido por la tasa de desempleo que ahora mismo se sitúa en el nueve coma cinco

si hablamos a nivel del estado español ha sido también el banco central europeo quien ha advertido que el desempleo real casi dobla al desempleo oficial mientras la tasa de desempleo oficial se encuentra en torno al dieciocho por ciento en el estado español el desempleo real se sitúa alrededor del treinta por ciento repito el treinta por ciento

de desempleo países como por ejemplo estados unidos diseñaron una nueva metodología para estimar una tasa de paro

mejor la realidad del siglo veintiuno y este método consiste en calcular nuevos indicadores a partir de la tasa de paro oficial y para ello se añaden distintos indicadores con el fin de contabilizar como parados a aquellas personas que se encuentren en tres grupos en los siguientes tres grupos el primero el primer supuesto las personas que aunque quieran trabajar no buscan empleo porque creen que no van a encontrarlo y eso grupo es conocido

las trabajadoras desanimadas el segundo supuesto se incluyen aquellas personas que no buscan empleo porque están esperando uno que se ajuste

a su cualificación o que están esperando una convocatoria de ope que han sido despedidas pero que no confían en ser readmitidas en su empresa

y a estas personas de este grupo se les denomina activas potenciales

y último lugar se incluye también a todas aquellas personas que trabajan menos horas de las que les gustaría es decir contabiliza a todas aquellas personas que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa tal y como ellas querrían

encuentran satisfechas sus necesidades de trabajo en el mercado laboral y por ello es razonable incluirlos como demandantes de empleo aunque no sean estrictamente personas desempleadas y además conviene remarcar que las principales afectas en este grupo

si añadimos estos tres grupos de personal al indicador que mide la tasa de desempleo hace de este un indicador más realista un indicador que nos da como resultado lo que muchas personas expertas denominan como tasa de paro real

jornadas completas mensual o anualmente pues tenemos

en una tasa de paro real y antes hablaba de la tasa de paro real de europa y de españa pero euskadi

aquí presente se propuso como objetivo reducir la tasa de desempleo por debajo del diez por ciento y algo que como ya hemos dicho en otras ocasiones pues se conseguirá independientemente de las acciones de ese gobierno

pero ante un mercado de trabajo precarizado como es el que existe en pleno siglo veintiuno es necesario contar con una medición de tasa de desempleo del siglo veintiuno

qué pasaría si midiéramos el desempleo con un indicador

se lo digo en un momentito y no son datos que nos inventemos en elkarrekin podemos

y citaré así datos de la propia encuesta de población activa llevada a cabo por el

el gobierno vasco dice que la tasa de desempleo oficial es del once coma siete por ciento en el tercer trimestre de dos mil diecisiete

si miramos cuál es la tasa de desempleo real en euskadi es del veintidós coma seis por ciento repito la tasa de desempleo real en euskadi es del veintidós coma seis por ciento diez coma nueve puntos superior a la oficial

siete coma ocho puntos son causa de trabajadores y trabajadoras con empleo a tiempo parcial involuntario es decir personas que no encuentran

euskadi pasaría de ser la segunda comunidad autónoma con menor tasa de desempleo a ser la séptima comunidad autónoma con menor tasa de desempleo del estado español

que la rioja que cataluña y que madrid sinceramente y lo digo de manera totalmente

creo que es hora de dar pasos adelante para conocer mejor la realidad de nuestro país y poder ofrecer a la ciudadanía soluciones adaptadas a nuestra verdadera

para medir el desempleo en un mercado laboral del siglo veintiuno no podemos usar indicadores del siglo veinte y desde elkarrekin podemos

ser útiles para mejorar la vida de las personas en euskadi y eso pasa sin duda por conocer la realidad de nuestros mercados de trabajo y por conocer la realidad

porque así es así y solo así como podremos implementar las políticas públicas de empleo óptimas que mejoren la vida de nuestra ciudadanía

un tanto rara extraña a lo mejor por malentendidos que ha podido haber

mimbres para llegar a un acuerdo no se llegaba a materializarlo pero finalmente bueno pues tras un ejercicio de generosidad de entendimiento por parte de todos y todas

eso es lo que nos contenta y sin más agradecer al señor aguirre a la señora larrion a la señora castelo que por fin hemos conseguido llegar a un acuerdo y además agradecer al señor ruiz de arbulo por su disposición desde un principio para votar a favor de la transacción a la que hemos llegado

veintiocho coma tres por ciento langabezi sariak jasotzen ditu beraz

porque hoy hemos venido a hablar de cómo medir la tasa de paro pero no para hacer un mero ejercicio aritmético estadístico sino que precisamente para avanzar en cuestiones de empleo y además creo que hay una cuestión básica que por lo menos en un punto anterior en el que se estaba hablando de los parados de larga duración ha aparecido cuando en un momento se puede ser parado de larga duración pero a su vez se puede ser joven ya porque son variables absolutamente independientes la una

son categorías que no suponen exclusión entre sí la cuestión y lo comento aquí porque

sí que realmente una variación en el marco conceptual sobre las variables de empleo porque pone sobre la mesa considerar variables que hasta ahora se consideraban mutuamente excluyentes como que no lo son tal si vemos las clasificaciones como también nos lo exponía el señor bollain

se considera que está ocupada si tiene un empleo o si está en situación de desempleo y si no pertenece a la población inactiva con lo cual dentro de la categoría de empleados parece que estar empleado es mutuamente excluyente con ser desempleado eso ha sido así hasta ahora

la cuestión es que eso ya no está nada claro es decir que la respuesta empieza a ser que no porque existen ya categorías que hablan de empleo de calidad y de subempleo

porque cuando se dice también aquí muchas veces en discursos políticos que se está generando empleo de calidad por qué porque lo dice uno necesitamos evidentemente indicadores que digan

y pone cuatro indicadores el índice ingresos es decir el de salarios

el índice de la calidad intrínseca del empleo y el índice de calidad del tiempo de trabajo que incluye también

con lo cual y efectivamente también yendo a los datos del primer trimestre de dos mil dieciocho se podría decir que el empleo que se genera en la comunidad

pues la verdad es que no porque al menos incumple varios de los índices porque en el primer trimestre el noventa coma cinco por ciento de los contratos fueron temporales con lo cual incumple uno de los criterios de calidad y dos quintas partes fueron a tiempo parcial con lo cual también se incumple

es decir que tal y como nos comentaba el señor bollain hay una cuestión que es el subempleo una persona puede estar considerada

otro empleo que cumpla todos los requisitos que tendría que tener un empleo de calidad existe el subempleo por insuficiencia de horas y ocasional

tenemos diferentes tipos de subempleo y efectivamente estamos de acuerdo en que necesitamos indicadores eficaces

que analicen perfectamente el empleo la calidad y el desempleo

bat egiten dugu porque es de especial interés para cualquier sociedad precisamente analizar

por qué están inactivas y es especialmente importante en nuestro caso porque si tenemos casi ya un cincuenta por ciento en el último trimestre de población activa

muy importante y tal y como hay otros indicadores habría una parte de esta población inactiva que con unas adecuadas políticas de empleo podrían pasar a ser población activa es un porcentaje muy amplio y en estudios que se han realizado en otros países se consideran que

perfectamente dirigidas a estos colectivos por eso si queremos poner a las personas en el centro de las políticas habrá que dar pasos para ellos habrá que incorporar esta monitorización de las diferentes

dentro de la población inactiva para hacer políticas activas para cambiar de situación

sino a los parados marginalmente vinculados a la fuerza de trabajo o a los trabajadores desanimados edozein kasuan ere guk uste dugu gaur aitortu behar dugu

cuestiones vamos a debatir hoy a instancia de elkarrekin podemos una cosa concreta que es sobre las diferentes metodologías para la medición de la tasa de paro sobre eso

su proposición parte de una base que los socialistas compartimos y es que la medición adecuada de las variables económicas sobre todo las relativas a empleo es básica

de base al diseño e implementación de las políticas públicas que reduzcan las desigualdades y mejore la calidad

integral eficaz y eficiente añadiría yo y para eso es para lo que se necesita el tema de los indicadores por tanto

lo más completa posible sobre los principales aspectos económicos y sociales en los que se mueve el mercado de trabajo de modo que estos

la predicción y la toma de decisiones actualmente es cierto

es la encuesta de población activa que se viene desarrollando desde mil novecientos sesenta y cuatro y que cuenta con un diseño homogéneo

una encuesta que sigue la metodología marcada por la organización internacional del trabajo que ha hecho mención el señor bollain en su intervención y que ha ido incorporando a lo largo de los años cambios

sobre situaciones concretas existentes en el mercado de trabajo y que se iban viendo que eran necesario ir testando como podía ser el trabajo a tiempo parcial la formación

un futuro empleo entre otras cuestiones que son de las que se han ido modificando hasta los últimos años

protagonismo en estas estadísticas es la tasa de paro y aquí lo hemos visto porque ha habido un baño de datos

interesante verdad es un concepto sobre la que en estos momentos los expertos en la materia en la materia estadística están manteniendo un debate sobre la metodología

de paro que se utiliza actualmente las estadísticas que se elaboran sobre todo

y prescinde de algunas situaciones que podrían ser consideradas también como paro que es un poco por donde ha ido usted en la argumentación señor bollain el debate se ha hecho podríamos decir que popular

meses en tanto que algunos organismos los han mencionado también han incluido algún tipo de cálculo alternativo en los análisis que realizan no una metodología concreta pero sí

su propuesta la propuesta de elkarrekin podemos nos pide en su propuesta original que miremos a la metodología que utiliza allende los mares

que de forma genérica y sencilla usted ha hecho un recorrido consiste en contabilizar el paro a partir de la definición oficial que es la que se utiliza también aquí en europa y la que utilizamos

añadiendo determinados colectivos que actualmente no son considerados como parados

inactivos disponibles o trabajadores a tiempo parcial involuntarios

una definición de tasa de paro pues más ampliada es cierto y eso se lo tengo que reconocer que el conocimiento de otros factores puede resultar de interés conocer la fuerza del trabajo

de ese colectivo de inactivos que curiosamente no se comporta de igual forma el porqué de su expulsión del mercado de trabajo si es un tema de proceso de trabajo de desacople de perfiles de cualificación

pero valorar qué medición del paro es mejor o más adecuada no resulta sencillo y no está exenta de ciertas dosis de subjetividad por eso creemos que previamente

otras cuestiones tales cómo qué cuál es la realidad o qué realidad es la que queremos medir desempleo desocupación inactividad trabajo infrautilizado o para qué queremos utilizar dicha información desde luego no para el debate desde una tribuna

para el imagino adoptar determinadas políticas públicas de ahí que tanto el grupo nacionalista vasco como el grupo socialista enmendáramos su propuesta porque daba por válida ya sin más

y propusiéramos de forma conjunta que previo a cualquier variación en la metodología o en la forma de hacer y realizar y computar

que nos ofrezca los elementos de juicio necesarios para incorporar o no a las futuras encuestas este tipo de ampliaciones en la tasa porque hay que tener en cuenta y eso tampoco hay que olvidarlo que actualmente la definición de paro que se utiliza

colectivo e decir personas desocupadas que buscan trabajo y no lo encuentran así de sencillo

con la del resto de países de nuestro entorno próximo pero esto que les digo

ya que captan otra parte de la realidad que no recoge la definición actual de hecho los socialistas creemos y creo que compartimos tanto con la señora larrion como con usted

es muy recomendable para medir la salud laboral del mercado de trabajo ustedes han hablado de calidad en el empleo o de la salud del mercado de trabajo existen informes recientes además de los que ha mencionado la señora larrion que recogen que existe una vinculación mayor

entre mayor riesgo de pobreza y el trabajo a jornada parcial fundamentalmente en relación lógicamente con lo que significaría un salario anual

a través de las contrataciones parciales y temporales parcialidad y temporalidad que nos ha ocupado en este parlamento en otros debates y que seguirá ocupándonos

el inicio de mi intervención de que el objetivo de las estadísticas es que nos proporcionen una información sistemática lo más completa posible que sea útil para poder tomar decisiones

una propuesta para que a partir del tercer trimestre ya del dos mil dieciocho se publicara por el eustat una información sobre el subempleo ese concepto que todos hemos convenido que es el de aquellas personas que trabajan a jornada parcial de forma involuntaria

hacia adelante y por tanto tendremos en este parlamento un estudio con respecto a la incidencia de la tasa de paro ampliada

estudie las diferentes metodologías que existen no solamente la que se nos mencionaba en la iniciativa sino las que existen actualmente para ver si podemos incorporar en el año dos mil diecinueve

nueva información bueno pues congratularnos que hayamos llegado el señor bollain y yo a coincidir en una proposición transaccional agradecer la voluntad al resto de grupo que han estado también en esta y que sea esta la tónica que a partir de ahora pues lleve la actividad parlamentaria en esta cámara

hain zuzen ere biztanleria jardueraren arabera europar batzordearen erregelamendua erabiltzen du por lo tanto como decía la preocupación que usted ha traído aquí con esta iniciativa con esta pnl nos parece totalmente fundadas sino que compartimos plenamente la utilidad

que nos permitan afinar aún más la información en materia de desempleo nos parece en este momento especialmente importante realizar

visibilizar y evaluar la incidencia de nuevos modos de desempleo relacionados no solamente con la precariedad laboral sino también con el mercado laboral

por lo tanto con el fondo de la iniciativa no hay ningún problema desde el principio estábamos de acuerdo sin embargo sí es cierto que

sobre el modelo a utilizar porque como decía las estadísticas oficiales

se basan en metodologías europeas en reglamentos europeos determinadas por el ámbito europeo en el caso concreto de la encuesta de población

se utiliza una definición concreta de la comisión europea que es el reglamento

y que a su vez establece disposiciones de aplicación

del consejo de otro reglamento del consejo el quinientos setenta y siete barra noventa y ocho relativo a la organización de una encuesta

encuesta muestral sobre la población activa en la comedida por lo que respecta a la definición operativa del desempleo el cuestionario de la pra que se hace aquí en euskadi y que utiliza la

con rigurosidad los criterios de proporcionalidad y carga no excesiva para las personas encuestadas limitando las preguntas

a las personas a las que se hacen las encuestas y esto es el motivo principal por los que las preguntas del cuestionario se limitan a determinar una definición estándar en relación al mercado de trabajo

y por otra parte como ya se ha mencionado aquí por parte de la señora larrion por otra parte ha habido un gran trabajo realizado a lo largo de los últimos meses para preparar el nuevo plan vasco de estadísticas y

han estado trabajando en el anteproyecto de ley de este plan vasco y estos agentes expertos académicos usuarios también

de nueve meses entre mayo del año pasado mayo dos mil diecisiete y febrero de este año y

de analizar todos los detalles y las demandas que el nuevo plan va a exigir

de reflexión sobre las necesidades de nueva información nuevos datos estadísticos pues nadie ha planteado lo que

estudiar la tasa de desempleo ampliada determinada

no obstante como decía antes sí nos parece útil la información que usted reclama

instituciones grupos políticos partidos respuestas a nuevas problemáticas que están surgiendo en la sociedad de hoy en día otras formas de desempleo y creo que entre todos tenemos obligación y entre todas tenemos obligación de contestar

creo que logrado un amplio acuerdo que más o menos ha sido

pero bueno con esta enmienda transaccional que sin duda nos parece

las cuestiones que afectan a ese nuevo desempleo pues vamos a ir pensando entre todos en nuevas respuestas eficaces para contrarrestar estos problemas por lo tanto tenemos ya al gobierno vasco implicado

a este parlamento el departamento de empleo y políticas sociales entregará un informe que integrará los datos que eustat ha producido no produce informes ni puede hacer estudios simplemente produce datos y los informes los tendrá que hacer el departamento responsable que en este caso es el de empleo

y de políticas sociales y por otra parte y siguiendo bastante

ilusión o su deseo vamos a pedir a eustat que

para utilizar o ver de qué forma se podrían utilizar otras medidas

la tasa de desempleo ampliada y considerar la inclusión de estas preguntas adicionales en el cuestionario del año que viene beraz

muchas gracias señora presidenta lehendakari consejeros buenas tardes señorías buenas tardes a todos

en el que volvemos a hablar de empleo y yo creo que la iniciativa que el señor bollain en nombre del grupo elkarrekin podemos nos ha puesto esta tarde encima de la mesa es muy interesante

sí la iniciativa nos pareció muy buena había cosas que no compartíamos pero más que nada en la justificación previa

que votáramos y apoyáramos todos que decidimos no enmendarla porque creíamos que podía salir adelante simplemente tal cual usted no ha cejado en su empeño y ha conseguido gruñir un acuerdo de todos los grupos que desde luego vamos a apoyar porque es positivo hay conceptos que yo no acabo de compartir pero bueno le intentaré explicar cuáles son y por qué no los compartimos desde nuestro grupo entiendo que

manteniendo los mismos índices de medición de la situación del mercado laboral para ver en qué estadio nos encontramos y hacia dónde va la evolución en este momento estamos en un momento de crecimiento económico por encima de la media europea por encima del tres por ciento del pib anual

generación de nuevas afiliaciones a la seguridad social descenso de la tasa de desempleo en unas cantidades bastante importantes si a treinta y uno de mayo nos dicen que la media de estos cinco primeros meses del ejercicio dos mil dieciocho se están creando mil setecientos empleo diarios y miramos hacia atrás y vemos que hace

empleos al día se le ha dado la vuelta y ahora vamos en una senda positiva en el último mes

doscientos cincuenta y dos mil doscientos siete nuevos afiliados a la seguridad social el trabajo es bueno lo que nos queda por hacer en mucho

españoles que quieren trabajar y no lo pueden hacer pero como la maquinaria ya está en marcha y se está generando empleo podemos fijarnos

que es algo importante y ahí es donde no comparto parte de los análisis que usted hace en su iniciativa sí entiendo que podrían considerarse personas desempleadas aquellas del último grupo al que nos hemos referido que efectivamente quisieran trabajar a jornada completa pero no lo pueden conseguir

que se pueden considerar desempleados no así yo no considero desempleada a una persona que tiene un trabajo

temporal y le gustaría que fuera indefinido yo esa persona no la considero desempleada de las misma manera que de esos doscientos cincuenta y dos mil nuevos afiliados a la seguridad social si hiciéramos una encuesta

les gustaría tener un contrato fijo o una retribución salarial por encima de la que tienen con ese nuevo puesto de trabajo pues podríamos decir que de los doscientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta mil

hay que mantener los índices que teníamos pero creo que es muy interesante que tengamos unos índices nuevos que nos permitan efectivamente analizar qué nichos de la población

qué colectivos están trabajando en unas condiciones que consideramos que no son las óptimas para que las administraciones públicas fundamentalmente puedan dirigir ahí sus empleos

se cumple va a tener un efecto inmediato le voy a explicar por qué señor bollain

usted en su acuerdo ha conseguido con el gobierno que

de empleo y políticas sociales junto con el eustat realice una serie de medición de los índices

esa tasa de desempleo ampliada creo que le llama usted en su iniciativa

si se hace con los trabajadores del eustat y no se externaliza que

porque es a tiempo parcial y con una retribución absolutamente injusta consideren mejorar inmediatamente sus condiciones y podríamos volver a sacarlas de ese colectivos de empleo precario que mantiene el gobierno

mucho más importante de lo que usted cree yo creo que son necesarios esos índices son muy importantes para ver cómo evoluciona durante los próximos meses el mercado de trabajo durante este año y el año que viene para ver si las políticas que se han puesto en marcha efectivamente han sido positivas o hay que cambiarlas y si las políticas activas de empleo que se tengan que llevar a cabo desde lanbide en este proceso

puestos de trabajo y que ayude a unir las necesidades de las personas que quieren trabajar con las de las empresas que necesitan trabajadores en buenas condiciones en condiciones dignas de trabajo

me parece que es muy importante muy interesante y por eso desde un principio hemos considerado que había que apoyar esta moción y eso es lo que vamos a hacer

buenas tardes señorías gracias señora presidenta señora consejera presentamos desde el grupo popular esta moción consecuencia de interpelación que hacíamos a la señora consejera de desarrollo económico e infraestructuras referente a la propuesta de bruselas de la comisión europea sobre el marco financiero plurianual y la política agraria común la comisión europea ha hecho públicas las propuestas legislativas para la reforma de la pac para el periodo dos mil veintiuno dos mil veintisiete

de la política agraria común a partir de dos mil veintiuno

europea relega a un segundo plano el carácter productivo el fomento de la eficiencia empresarial y los mecanismos de regulación de mercado esto no

para la comisión europea lo importante está en las medidas cosméticas de supuesto carácter social y medioambiental pero es que

como si fuera poca la que ya existe cuando todos los estados miembros y el propio sector piden simplificación y socaba un principio básico como es el de la unidad de mercado atacando el carácter común

la comisión europea plantea además una nueva arquitectura medioambiental que además de ser más compleja

a la actividad agraria de las explotaciones en cuanto a los mecanismos de gestión de mercados la comisión europea persiste en el desmantelamiento no aporta medidas para salvar oscilaciones de mercados que pueden sufrir los agricultores y ganaderos en determinados periodos

la comisión europea insiste en vendernos medidas de carácter cosmético como les decía como es la figura de la agricultor genuino

medida que está más que en entredicho y que se duda de su legalidad es muy difícil para la actividad agraria responder a más obligaciones

esto sencillamente supone el cierre de un porcentaje de un alto número de explotaciones todos los agentes y organizaciones que trabajan en el medio rural

de este ámbito tanto el forestal el rural agrario el ambiental sindical mujeres rurales agricultura ecológica entidades locales

ante la nueva pac y resumiendo en dicho documento se considera que la pac es una política clave desde el punto de vista

y ambiental y que debe tener como objetivo fomentar la producción sostenible de alimentos generar actividad y cohesión socio económica en las zonas rurales

contribuir a luchar contra el cambio climático lograr la preservación del medio ambiente y los recursos naturales mantener la calidad de vida

en el mundo rural y frenar su despoblamiento y para esto es necesario que la futura pac sea correctamente diseñada con unos objetivos revisados que responda a las demandas de los ciudadanos a la magnitud de los retos mencionados anteriormente y que esté dotada de un presupuesto sólido y adecuado a los

pero señorías en este nuevo gobierno de españa que tenemos de presidente no electo tenemos la diseñadora de esta propuesta diseñadora como ministra de economía la señora nadia calviño

la factoría calviño le llaman y de aquí salió la propuesta de reforma de la pac que ya lleva su nombre

propuesta que plantea recortes para la pac y la política de cohesión y aumentos en otros capítulos de gasto el brexit obliga

lo decía muy fácil la pac y la cohesión el resto

como les decía la máxima

es quien ha de diseñado esta pac y es sorprendente cómo va a ir a bruselas este gobierno a defender lo que estamos proponiendo mantenimiento de la pac

sorprendente ante esta propuesta de pac que teníamos españa y su

irlanda finlandia y grecia acordaron una declaración

adecuada de la pac la pregunta es mantendrá el gobierno sánchez el apoyo a esta declaración esta declaración decía que

gracias a la pac la unión europea debe ofrecer un suministro seguro de productos agrarios que responda a los máximos estándares sanitarios y medioambientales a costes razonables que permitan a los productos europeos sean competitivos en el comercio internacional constatan

se expone al aumento de la volatilidad de los precios mundiales

pero son conscientes de que el apoyo a la agricultura de la unión europea contribuye a limitar los efectos

en los mercados agrícolas vulnerables estos países también subrayaban que la agricultura europea debe hacer frente a nuevos desafíos principalmente ante las grandes expectativas de la sociedad en lo que se refiere al medio ambiente la lucha contra el cambio climático la protección de la biodiversidad y la salud lo que refuerza la necesidad de una reforma

esencial para apoyar esta necesaria transformación de las explotaciones agrarias

a estos retos y desarrollar su residencia aumentar su competitividad y garantizar el relevo

insisten en la necesidad de garantizar una competencia leal entre estados miembros y de alcanzar un equilibrio justo entre los objetivos y las herramientas comunes también la flexibilidad necesaria en su aplicación nacional deberán establecerse un nivel común

ayudas se tendrá que prestar la máxima atención a los retos de simplificación de ambos pilares y en particular de la condicionalidad

en todos los territorios de europa de esta forma contribuye a la vitalidad de las zonas rurales incluidas

las islas y la integración europea lamentan profundamente que la comisión haya propuesto para el futuro marco financiero una reducción del presupuesto para la pac recuerdan que esta disminución en ambos pilares supondría un riesgo sin precedentes para la viabilidad de las explotaciones agrarias europeas para los ingresos de los agricultores y para su capacidad

de una alimentación saludable sostenible asequible y de calidad y solicitan que se aumente el presupuesto de la pac a su nivel actual

nosotros presentamos una moción después de la interpelación y hemos llegado tras la enmiendas que los grupos han presentado a una enmienda de transacción en la que décimos lo siguiente

como actividades imprescindibles para el país vasco tanto por su contribución al medio ambiente

sociales y culturales de nuestro entorno rural y de ser elemento de conjunción con otras actividades como el ocio en la naturaleza el turismo o la producción energética renovable

a que en colaboración con las diputaciones forales avancen en el desarrollo de políticas que impulsen un sector agroalimentario mirando innovador de calidad sostenible y con reconocimiento social promocionando la incorporación de jóvenes y el papel de las mujeres en el medio rural desarrollando mecanismos

al sector y en defensa de los intereses de nuestros agricultores ganaderos y forestalistas también instamos al gobierno vasco a que trabaje y debata con otras administraciones competentes así como con los agentes del sector para conseguir un esquema de paz no sujeto a reformas permanentes que mantenga los dos pilares actuales

de desarrollo rural cofinanciado por la unión europea y por euskadi

como mecanismo de apoyo ante posibles crisis de los mercados para que el sector sea económicamente autónomo joven y

en el cuarto punto instamos al gobierno vasco a realizar un nuevo documento de actualización de trabajo que ya se hizo en su día del coste de la nueva agricultura en el país vasco que se publicó en el dos mil seis que fue financiado por el gobierno vasco y editado por eusko ikaskuntza

y que será presentada en la comisión de desarrollo económico e infraestructuras

que plantearon tanto el grupo podemos como eh bildu que no hemos recogido en esta enmienda de transacción porque creo que hemos llegado a un acuerdo de mínimos se pueden poner muchas cosas ya ven los acuerdos que se han firmado

miembros que les he citado como entre distintos agentes del sector pero creemos que la enmienda que hemos planteado es una enmienda que recoge los principios básicos que debe tener la pac y su aplicación

así como esa actualización de un trabajo tan interesante como es los efectos que puede tener para esta comunidad autónoma o el coste que puede tener la no actividad agrícola ganadera y forestalista por lo tanto señorías

moción la enmienda que hemos llegado a consensuar con el grupo nacionalistas vascos y socialistas vascos me gustaría que tanto eh bildu como el grupo podemos si no todos los puntos algunos los puedan votar y nada más muchas gracias

eman behar die cuál es la agricultura y la ganadería que queremos en nuestro grupo que queremos en nuestro país una agricultura y una ganadería digna productiva sostenible y para todos y todas digna para que los agricultores y agricultoras puedan tener una calidad de vida y unas condiciones de vida y una forma de vida sostenible productiva para que puedan darnos los alimentos que necesita nuestra sociedad alimentos

y una agricultura y una ganadería para todos y todas que permita el acceso de los y las jóvenes

la pac solamente es la herramienta solamente es la herramienta para conseguir el objetivo

porque de lo contrario si no sabemos cuál es la meta la meta se puede convertir simplemente en cobrar las ayudas que es lo que ahora sucede la meta

es ver cómo nos repartimos las ayudas no cómo conseguimos una mejor ganadería y una mejor agricultura aquí en euskadi y ese es el fracaso de la pac ahora mismo el fracaso de la pac es que no ha conseguido cambiar nada y sin embargo lo que ha conseguido es

el interés económico que hace que quien más tiene

a día de hoy en españa y en euskadi también quienes cobran más de la pac son por un lado las grandes empresas del sector de la alimentación

o zumos del mediterráneo pero en euskadi también en euskadi quienes más se llevan de la pac son que es el gobierno cune bodegas faustino el coto de rioja casalbor

bodegas eguren esto no es la carta de un restaurante esto es

en ayudas de la pac son quienes más cobran en todo euskadi y además de las grandes empresas del sector de la alimentación tenemos a los grandes terratenientes

es la casa de alba la duquesa de alba más de tres millónes de euros y después juan abelló

pero en euskadi tenemos también tenemos nuestros terratenientes propios

en araba es una empresa que tiene la sede en la calle san antonio de vitoria gasteiz

en gipuzkoa del pago básico es una empresa que tiene la sede en la calle miramar de donostia san sebastián

es una empresa que tiene la sede en la calle gran vía y la segunda

esos son nuestros agricultores y agricultoras y entre los diez primeros de bizkaia cinco

en euskadi y esto no es lo que queremos esto no es lo que quiere nuestro grupo nuestro grupo quiere que cobren quienes tienen que cobrar a día de hoy las mujeres solamente cobran el treinta y uno por ciento de las ayudas de la pac y los jóvenes ni si quiera eso

del terreno en el que trabajan y por lo tanto no cobran de la pac eta hori ez da guk nahi dugun

como he dicho es solamente una herramienta para construir la ganadería

que hasta ahora no se ha podido construir la pac

hay que reformarla hasta ahora solo ha servido para que quienes más tienen acaparen tierra semillas y subvenciones en un borrador del reglamento de la reforma de la pac actual se introduce una nueva definición que es muy llamativa es la de verdaderos genuinos o reales para nosotros y nosotras en elkarrekin podemos los agricultores y agricultoras verdaderos genuinos y reales son las agricultoras que promueven la igualdad

y son las pequeñas y medianas explotaciones que son la mayoría de las que existen en euskadi y lamento que una buena propuesta una buena moción del partido popular

donde se da paso a los forestalistas y a una serie de cuestiones que no tiene nada que ver

que desde luego nuestro grupo defiende por lo tanto no vamos a poder apoyar esa transacción y hemos tenido que llevar una transacción alternativa que sí satisface nuestras

y nuestros deseos muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

bai arratsalde on eta eskerrik asko tejeria andrea quería ser positiva pero no me lo has puesto nada fácil compañero

para no estar de acuerdo con el gobierno recién estrenado en españa

ondorioa eta gainera etorriko direnak ere bai les prometo que no quería hablar de la pac que no me gustaría ni siquiera hablar de ella no porque no sea necesaria porque

pero está visto que seguiremos hablando de ella por mucho tiempo y no por los beneficios que está trayendo al sector hoy para el sector la pac no tiene más significado que dinero

que trapichear incluso con derechos con derechos que no están unidos a la producción sino a la propiedad realmente es penoso empezar así por eso hoy he intentado venir positiva pero no creo

el modelo al que nos ha llevado esta pac es absolutamente desastroso pero es que no lo digo yo estamos en un libre mercado especulativo en un sálvese quien pueda el sector ahora mismo miro igual hacia álava pero es así está absolutamente descentrado

ellos verán desaparecen las medidas de los controles del mercado lo hemos vivido en primera persona ya han desparecido la cuotas lácteas han desaparecido también las cuotas de la remolacha

si liberalizamos esto qué nos queda precios bajos por los productos y esto la pac lo solamente lo pone encima de la mesa sino que lo asume y lo da por hecho

y dependencia no me gusta mucho la palabra dependencia me gusta más independencia pero lo que tenemos es un sector absolutamente dependiente de las ayudas

les digo que no quería hablar de ella y he encontrado un montón de sinónimos pero sinónimos que los vamos a entender absolutamente rápido ayudas subvenciones subsidios compensaciones asignaciones podría decir muchas más me quedo con limosnas este sector depende de la pac depende de estas limosnas limosnas para compensar los precios que no cobramos por lo que producimos algo tan sencillo

compensar aquellos alimentos que ya no son ni siquiera alimentos son materias primas

de pago verde además ahora estamos pintando de verde la pac

pero es algo tan sencillo como para hacer frente a lo que el sector no va a poder hacerlo por sí mismo hacer frente a los precios tan bajos que se están cobrando eso de que la pac va a cobrarlo por hacer cada vez mejor

porque europa siempre está ahí encima y una vez implantando medidas pero

y de este medio rural que se desangra además ya lo he dicho un sector dependiente

estamos ante una sangría de personas que trabajan en el campo cada vez menos personas

a una sangría de alimentos ya no sanos y locales de alimentos y a una sangría yo creo que de coherencia al fin y al cabo la nueva reforma de esta política agraria común

la pregunta es si lo está consiguiendo si esta pac ha sido efectiva desde luego podemos decir que efectiva no ha sido y esperemos que sí lo sea hoy importamos y exportamos alimentos como mera mercancía como meras materias primas

algo que es tan sencillo pero tengo que decir tengo que reconocer que la pac ha

que como poco impresiona no voy a hablar de las empresas porque esos datos que acabamos de oír que las sedes las tengan en centro

son jubilados eso quiere decir que si la pac apuesta por nuevas incorporaciones por mujeres y por jóvenes

ni seguir trabajando y cobrando iba a decir una burrada pero no llegan a mil euros de pensión después de haber estado labrando toda la vida es un poco

les estamos quitando el derecho a jubilarse al sector es la leche y voy a hablar de otro tema tabú que son las rentas

hasta la tierra a qué precio se puede alquilar una hectárea para poner cereal a ver si saben

que nadie sabe a lo que cuesta la tierra que se están pagando unas rentas desorbitadas y que se está especulando con esos derechos que nadie los puede tocar pero están nadie los puede ver pero existen y por qué existen esos derechos porque necesitamos cobrar la pac

pero que seguramente no nos van a gustar a todos pero desde euskal herria bildu sí que vamos a tomar medidas desde luego vamos

y si de verdad nos creemos un sector estratégico no tenemos más remedio que afrontarlo y que explicarlo efectivamente

al contrario está unida a las hectáreas a la propiedad a la extensión a la agroindustria a los mercados cuantos más derechos tienes más cobras es muy fácil de explicar no voy a seguir por ahí voy a darle la vuelta ahora voy a la parte positiva porque también la tengo nosotros

pero no entiendo la transacción que no han aceptado yo ayer por la noche lo intenté mandé un intento de acuerdo porque veía con más medidas concretas y la respuesta fue no no ya está acordado bueno agradecía y agradezco de verdad al pp al partido popular la intención pero no entiendo este acuerdo que

no dice nada apoyar al sector no sirve de nada sí podemos hacer una declaración institucional como hicimos la semana pasada pero no vamos a ningún sitio saldrá una declaración de intenciones van a salir unas palabras bonitas pero la realidad es que todo se decide ahí arriba que la producción de alimentos ya no es prioritaria

o mucho peor en manos de esas empresas que tienen la sede aquí en la calle san antonio que el parlamento vasco muestre su apoyo es algo simbólico para mí no sirve de gran cosa que se reconozca la funcionalidad del sector pues vale

que las administraciones avancen y se coordinen no hacen falta proposiciones no de ley es su trabajo para eso están que se negocie la pac en europa pues aquí cada uno es verdad que con no tener sus responsabilidades y tendría que

en la tierra aquí abajo y es verdad que el último informe que decía que se mida el peso del sector primario

la apuesta por el sector tiene que ser seria tiene que ser concreta tiene que ser ágil yo creo que

lo que estamos debatiendo hoy así que nuestra transacción la tengo aquí pero no voy a entrar a leerla entera

de jóvenes de mujeres claro de producto local de revisar la nueva política agraria común

existía y sabemos todos que existían fondos de compensación para una caída grave lo estamos planteando parece que no interesa bueno también instamos al gobierno de españa por eso ahora me sorprende que con esas novedades de gobiernos

de los y las personas agriculturas voy a ir acabando

modelo agroganadero con estabilidad sin especulaciones con un valor añadido reconocido multifuncional claro quién va a gestionar los montes quien va a gestionar el territorio si no es el sector primario los planes estratégicos están muy bien pero solo hay que

acudo a planes estratégicos pero me gustaría que sirviesen de algo y que se pongan

presidenta señorías me parece oportuno que hoy hablemos de la política

venimos haciéndolo desde hace bastante tiempo lo vamos a seguir haciendo este mismo mes además de contar con los europarlamentarios de todos los grupos políticos de esta cámara para hablar del futuro de europa tendremos un pleno

hacer lo mismo sobre el futuro de europa europa necesita repensarse y efectivamente esta es una de las políticas que tienen importancia importancia en nuestro país importancia en el conjunto de la unión europea

europa se está redefiniendo en estos momentos la crisis económica que hemos vivido que todavía no hemos salido de ella el euroescepticismo que tanto

varios países de la unión europea el brexit todos estos elementos han cuestionado de una forma notable la europa de la que veníamos y exigen una redefinición de la europa hacia la que queremos ir por lo menos los que somos

sin ningún tipo de condición sino absolutamente convencidos de que la única forma de mantener el modelo social económico político de libertades

hoy en el conjunto de los países europeos solo será posible su sostenimiento y mejorarlo si lo hacemos en el marco de una unión europea y desde luego no si vamos reduciendo

político económico y social por lo tanto todos estos cuestionamientos de la europa actual llegan a la ciudadanía la ciudadanía también se pregunta más veces de las que debiera qué es la europa de hoy hacia dónde caminamos en qué medida protege al ciudadano y le da oportunidades y obviamente a esto tenemos que responder como he dicho los socialistas queremos

queremos más gobierno europeo queremos más competencias queremos más recursos más presupuesto queremos más políticas universales pero obviamente eso habrá de pasar porque haya también más cesión de soberanía

no haremos más europa reivindicando cada uno su parcela sino que haremos más europa si vamos a una gobernanza común y si vamos a una política

en favor de esa europa de conjunto a la que nosotros desde luego sí apoyamos

si queremos tener una política europea mejor agrícola social económica y fiscal debemos de tomar opción y este parlamento hoy a iniciativa del grupo popular nos propone que lo hagamos y nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento inicial que ha hecho

la iniciativa y la enmienda transaccional salen en favor al sector agrícola y ganadero salen proteger el medio ambiente de la economía rural del empleo de la alimentación de los jóvenes de las mujeres por lo tanto la iniciativa y la enmienda transaccional

estabilidad y una mejor política económica y social para el sector necesitamos que haya una visión de futuro y de ayuda en el presente y sobre eso es sobre lo que estamos pronunciándonos hoy en este parlamento

se apuesta por asentar y mejorar las poblaciones y sus funciones en el mundo rural es decir todos estos elementos están en la propuesta que

creo que con mucha aproximación y mucha coincidencia también con los otros dos

haciendo aquí es evidente que la pac necesita de muchas políticas y de muchas reformas y que hay muchos aspectos de los que se plantean aquí por todos los grupos que tienen que ser objeto de mayor rotamiento pero también es evidente y tengo buena constancia de ello porque he tenido la oportunidad

con empresas de todo tipo del mundo agrícola y del mundo ganadero y desde luego no hay ni una sola fisura en el conjunto del sector agrícola y ganadero para pedir que no haya recortes en la pac que se mantengan los recursos que se doten de nuevos recursos tras la salida del reino unido y la reducción de presupuesto que implica

no aporte al conjunto de la unión europea y por eso yo creo que hoy conectamos con el sector con el sector ganadero y con el sector agrícola cuando defendemos que se mantengan esos recursos que la nueva financiación que se tiene que resolver para los próximos años

que sostenga las rentas agrícolas y ganaderas que sostenga todos los elementos que van añadidos a ella y yo creo que aquí con este planteamiento político con esta enmienda transaccional sí conectamos de pleno y de lleno con este sentir que hay

que la enmienda transaccional a la que hemos llegado es positiva da un avance implica un compromiso de este parlamento y por eso yo creo que hoy

reforzado este parlamento y saldrá reforzada esta política con el debate que estamos haciendo

sé que es una hora ya dura no están sus señorías acostumbradas a estos horarios

entretenerlos durante el tiempo que me corresponde para que el tedio no se incremente

murriztu dezaketenaren finantzazioa obviamente la consejera tapia explicó que difícilmente puede el gobierno vasco

y cuando el esquema de reparto de fondos se hace desde el gobierno español cuando entendemos mucho más eficaz el debate directo con bruselas no solo para ajustar el programa de desarrollo rural

unos presupuestos que nosotros entendemos más ajustados a nuestra realidad y a nuestra capacidad inversora pública y privada pero la realidad

ha venido buscando el consenso a favor del sector primario el verdadero afectado no solo por la previsible reforma de la pac previsible todavía

el sector primario es el afectado por la globalización el sector primario es el afectado por el arrinconamiento que otros sectores y los propios ciudadanos hacemos de él y vengo en principio ya iremos viendo vengo en positivo y no a hablar de pac

porque tampoco es un problema nuevo lo que le está ocurriendo y echando la mirada atrás ya en mil novecientos noventa y dos

plan que supuso una ruptura con el método tradicional de hacer política agraria y es el primer plan que introduce todas las externalidades que suma el sector primario vasco y desarrolló la diferenciación de la calidad la necesidad de la industria agroalimentaria como tractora y como dar

planteaba nuevas alternativas para el sector agrario como el agroturismo y se tomaba muy en serio la conservación de la naturaleza como un planteamiento de coherencia con el sector primario

además de promocionar el necesario desarrollo rural para hacer atractivo un mundo que ya entonces se vaciaba y sigue vaciándose digo esto

por parte de la administración y nada más lejos de la realidad adaptarse a los cambios imaginar proponer y hacer se ha hecho mucho y no es que hayamos confundido molinos con gigantes es que muchas veces la política agraria es que los molinos y los gigantes vienen juntos también en el primer lustro de este siglo

se empezaron a preocupar muy seriamente por el problema fundamental del sector primario vasco que es la falta de relevo falta de relevo que por cierto también ocurre en muchas zonas de europa y se trataba de darle la vuelta al tema y conseguir garantizar que el saber hacer la agricultura y ganadería se transmitiera entre nosotros

siguiera dando unas cifras que no relegaran al sector agrario a la irrelevancia en aquella época se hizo

en el que por primera vez se llamaba a participar activamente del sector primario vasco a todas y todos los jóvenes vascos y no solo a los que provenían del sector agrario del mundo rural

herritarrek herri kontzientzia dutelako hori da klabea en junio del dos mil seis el departamento de agricultura del gobierno vasco con el objetivo de alertar sobre lo que estaba ocurriendo

o lo que supondría la desaparición del sector agrario el estudio hizo la valoración económica del sector agrario pero además de calcular su aportación en alimentación y madera

sumó las aportaciones de las externalidades que aporta el sector primario sector que ejerce la multifunción económica ecológica y social y las cifras resultaban

la agricultura esencialmente produce alimentos y eso ya en sí mismo le debería convertir en un sector estratégico ahora bien en el momento global actual que vivimos cualquier país puede prescindir de producir alimentos porque cualquier alimento se puede conseguir en cualquier lugar del globo

perfectamente se podría organizar la tierra para que a pesar del daño ambiental de los movimientos de los alimentos en determinados lugares se especializaran en producir alimento y en el resto consumirlos pero

ni será por ello vuelvo a repetir que un país que se crea país y en euskadi así lo creemos tenemos el deber de mantener nuestra capacidad de producir alimentos

tenemos que ser capaces realmente de producirlos pero el sector primario además de alimentos ocupa un enorme espacio lleno de bosques ríos praderas cultivos

un espacio que de mejor o peor manera han modulado de generación en generación

y no hay que olvidar que en euskadi existimos porque primero durante milenios fuimos agricultores ganaderos y forestalistas también

es cultura pero hoy es necesidad de futuro y de presente la agricultura es producción primaria

que estructura la producción primaria y le dota de valor añadido agricultura es producción forestal y el mantenimiento de bosques y cubiertas arbóreas agricultura es el mantenimiento de la biodiversidad agricultura es poblar el medio rural y evitar la concentración antiecológica en grandes núcleos urbanos

es una idea es una filosofía es un modo de entender el territorio la sociedad y el país horregatik guztiagatik uste dugu erdibideko hau positiboa dela

genuke podríamos haber apoyado la otra

como dos gotas de agua nosotros

y nosotros hemos entendido que la promotora la señora lópez de ocariz del grupo popular nos ha venido con una transacción que creo que ella ha dicho tener elementos mínimos comunes

porque esta moción merecía la unanimidad de esta cámara realmente la merecía y si una analiza con detenimiento las dos se parecen como dos gotas de agua pero bueno

que no ha tenido todavía tiempo de hacer nada y que no sé realmente no sé lo que ha hecho como directora de presupuestos en la unión europea pero que en la unión europea le puso el pp porque no vengo con ánimo discutiendi vengo con ánimo apaciguandi y por cierto solo

para cobrar la pac no hay que ser propietario hay que ser titular de la explotación que no es lo mismo

pero me centraría en los que solucionados permitirían avanzar más rápido en el resto de problemáticas esos problemas primigenios diría yo son la comentada falta de relevo generacional mayor implicación en la defensa de la producción agraria propia

para abordar estos problemas no solo deben hacer esfuerzo las administraciones que ya los hacen

no bastan premios prestigiosos revistas de divulgación o programas de e i te be hace falta que las superficies comerciales de alimentos distribuyan más alimentos producidos aquí

aquí y hace falta que los consumidores de aquí busquemos y consumamos más productos de aquí hace falta que cuando las agricultoras y agricultores expresen libremente sus críticas que es lo que curiosamente más aparece en público también hablen en positivo de pertenecer al sector hablen de que es un sector difícil como tantos pero con sus satisfacciones

no es que tengan que hacer falsas excelencias solo es alimentar elementos positivos de ser agricultora o agricultor que los hay seguro y muchos falta que cuando los empresarios hablan de miles de puestos de trabajo previstos en la industria

se haga un pequeño hueco a la necesidad de agricultoras y agricultores también falta que cuando en el parlamento

haga una declaración institucional no sé por ejemplo sobre las abejas

para las agricultoras y agricultores y por tanto también para las ciudadanas y ciudadanos no haya sonrisas o jetas de perder el tiempo en fin salvar la agricultura no es responsabilidad de unos o de otros es algo de todas y todos

si queremos que nuestro país siga siendo país la agricultura es estratégica

hagan el esfuerzo de pensar que podría serlo y verán como enseguida les sale que es estratégico en resumen la agricultura en esencia es el arte de saber esperar

la defensa de la agricultura en cambio no le queda mucho tiempo y su defensa no es de agricultores
o administraciones que también es de todas y de todos muchas gracias eskerrik asko tellería

señor becerra le ha dicho el señor tellería la pac no exige ser propietario ser titular y se arriendan hectáreas se pueden arrendar y si no tienen se pueden arrendar con derechos o sin derechos

el que arrienda luego se queda con los derechos vale y los precios hasta donde yo sé

hay especuladores y usted conoce algunos y yo también

al parlamento por ejemplo verdad o sea que aquí

es cobrar la ayudas oiga pero si estamos todos los días en esta cámara y repasamos el presupuesto

no hay actividad económica en esta comunidad autónoma que no tenga ayudas por qué no puede tener ayudas la política agraria y común los agricultores de la política agraria y común una gestión única para veintisiete estados miembros

del medio ambiente que está produciendo alimentos con una calidad y seguridad alimentaria

por qué se las niegan cuando estamos todos los días aprobando aquí a la ciencia a la investigación no hay sector económico que no tenga ayudas de administración

todo el sector económico tiene ayudas por qué se lo niegan ustedes ustedes no han entrado en la enmienda de transacción porque no porque han venido a hacer demagogia

nos propuso tachó agricultores ganaderos y forestalistas

quién hace que son los agentes principales y el único punto que no se recogió es un informe que nos pedía usted

un informe no había en su enmienda una propuesta novedosa para la actividad agrícola y ganadera no había para la incorporación de jóvenes que es

van a la agricultura los jóvenes que no van ha presentado usted alguna iniciativa ninguna

ninguna de qué hablamos a qué hemos venido aquí a hacer demagogia mire

son los principales protagonistas y destinatarios de la pac

dónde tiene cada uno ubicado su dirección de la explotación usted sabe la eficiencia que hay de servicios en el medio rural conoce conoce la eficiencia muchos sitios somos punto negro no tenemos internet

o sea dónde pone su residencia pues es un sitio donde tenga servicios claro

no he visto una medida para que lleguen todos los servicios al medio rural ni una sola medida las dificultades que hay en muchos puntos en rioja alavesa claro que hay dificultades muy importantes qué problema hay de que haya una gran explotación de vino tiene usted algún problema es actividad económica y puede haber grandes medianas y pequeñas y cada uno tiene su porcentaje de ayuda

pero qué problema tenemos con eso por qué no puede haber

por qué no puede haber sencillamente me parece

tan demagógico que es que me llama la atención me llama la atención señoría nosotros desde luego lo que queremos es una agricultura fuerte potente y que no se pierda la actividad agrícola y ganadera y por eso queremos que se vuelva a actualizar ese documento del coste de la nueva agricultura de la no

que es tan primario como la agricultura y la ganadería aunque a usted no le parezca porque también son especuladores no pues no son especuladores

ni agricultor ni forestalista para ser especulador

señora lópez de ocariz no le voy a entrar en ese juego en atención a la

encomiable y perfectamente defendible perfectamente defendible su problema y por eso se enfada aquí tanto es que en lugar de intentar

cuando el gobierno le ha colado su mensaje lo curioso es que cuando hemos intentado tanto eh bildu como nosotros que hemos hecho cada uno una propuesta quien nos ha respondido que no no ha sido usted ha sido el gobierno y la iniciativa era suya

era perfectamente defendible lo único que quisimos meter nosotros nuestro grupo fue

primordial de la agricultura y la ganadería la producción de alimentos en su transacción no aparece nada sobre la producción de alimentos el señor tellería ha hecho un discurso también encomiable

compre productos vascos no han metido ni una sola palabra sobre la producción de alimentos en su transacción ni una sola palabra y sí

de renovar el sector agrícola y ganadero con la introducción de nuevos jóvenes un párrafo completo y otro sobre la igualdad de mujeres y hombres fíjense

se aprobó se aprobó una propuesta sobre el desarrollo del estatuto de las mujeres agricultoras

hemos sido el único grupo que lo ha desarrollado y sin embargo

abstenernos porque no nos podemos negar a su transacción pero lo que no puede decir usted es que estamos haciendo demagogia el problema es que el gobierno le ha colado

junto a la de agricultores y ganaderos y yo taché las tres palabras para poner mundo rural simplemente por hacerle un favor

cuántas ayudas recibe el sector de la agricultura ecológica en euskadi del programa de desarrollo rural dos millónes sabe cuánto recibe el sector forestalista sesenta millónes

señora lópez de ocariz treinta veces más y a usted que defiende habitualmente mucho más que yo desde luego al pequeño agricultor y ganadero le han colado al sector forestalista

ya lo ha dicho el sistema agrícola es un modo de entender el país el modo de entender el país que tiene este país es dos millónes de euros para la agricultura

sesenta millónes de euros para el sector forestalista de los pinos y los eucaliptos y se lo han colado

pero también tengo que decirle que no es demagogia decir dónde están las direcciones de quienes cobran más de la pac porque el debate de aquí es

cobren más quienes más lo necesitan y quienes más lo merecen y que cobren menos quienes no lo merecen

en el centro de las principales ciudades cobran de media cuarenta y cinco veces más que la media de los agricultores y ganaderos de euskadi porque la media señores y señoras está en tres mil ochocientos euros y estas empresas cobran

de ellas y esta es la realidad por supuesto que

claro que necesitan como todos los sectores la cuestión es cómo se reparten esas ayudas cómo se reparten esas ayudas y usted ha hecho una buena propuesta y le han colado un sector que no necesita más ayudas que el sector que es el sector forestal y sin embargo

la distribución y la comercialización de alimentos que es para lo que está la agricultura y la ganadería para producir los alimentos que necesita este país pero como le digo lo que sí lamento es

que no nos vamos a oponer que vamos a abstenernos pues de alguna manera carguen las tintas contra un discurso que yo he hecho que desde luego no era contrario al suyo gracias eskerrik asko becerra jauna

hablando de la política agraria común oyendo de verdad barbaridades no quería hacer réplica pero yo no sé cómo lo hago tengo que volver a salir porque realmente me duele que hay cosas aquí que se han dicho que me duelen primero

efectivamente es que lo intenté no ha habido manera pero está claro por qué no ha habido manera porque estamos hablando de dos modelos absolutamente diferentes un modelo que apuesta por las personas

cualquier país puede producir alimentos efectivamente pero la tierra no lo va a aguantar

de manipulación y de especulación efectivamente falta relevo claro porque falta rentabilidad

da dinero nada más que eso tan sencillo el gobierno vasco claro que puede hacer cosas

de sostenibilidad de cosas verdes yo estoy harta de oírlo cofinanciemos el plan de desarrollo rural estará queriendo decir que estamos poniendo dinero a lo que llega de europa que de verdad estemos haciendo una puesta clara y hablando de un sector estratégico de momento

habla de filosofía de ideas de modo entender el país quién de esta cámara ha cogido una azada

el sector no se puede dirigir desde la administración y desde el sector hay que dirigirlo desde la tierra

no es un trabajo más es un modo de vida es así no son dos gotas de agua lo que decía señor tellería no no no yo he intentado concretar

estoy en contra de hacer demagogia del paternalismo de muchas veces que se vive en esta cámara y de realmente no dar pasos eficaces nada más eskerrik asko

creo que el interés de este debate está en defender y proteger que haya una política agraria común y que por lo tanto haya recursos suficientes para que se de esa política agraria común como se viene dando hasta ahora hace

la unión europea abrió este melón fundamentalmente a partir de la situación creada por reino unido en relación al brexit y

tres escenarios que se tiene que sustanciar en los próximos meses y que

del año dos mil veintiuno al año dos mil veintisiete en esos tres escenarios se planeaban mantener la situación actual y por lo tanto uno de ellos era

para poder sostenerla el otro escenario era recortar aproximadamente un treinta por ciento de los recursos y un tercer escenario era

la unión europea es que los estados pudieran implementar las carencias económicas que generan

de recorte presupuestario por la falta de entrada de recursos yo creo que de aquí podemos discutir la parte pero si no discutimos el todo probablemente nos estaremos

habrá política agraria común si esta no se deja en manos de los estados en manos de su implementación en la financiación porque esto probablemente desarmonizara todas las políticas agrarias y ganaderas

en los últimos años y que en parte se han podido sostener por esa política agraria común

debe de ser porque los presupuestos de la unión europea reciban más recursos para que reciban más recursos

deben de aportar más y esto no es algo que en la unión europea se puede resolver de forma tranquila porque hay quienes consideran que tiene que haber menos europa y quienes consideramos que tiene que haber más europa

por tanto menos gobierno por tanto menos política y por tanto menos competencias y quienes consideramos lo contrario este es el sentido de la aportación que nosotros hemos hecho aquí

más allá de que a su vez se aproveche para redefinir o plantear algunos aspectos puntuales pero el fondo el interés el fondo de este debate

que los gobiernos y en este caso el gobierno de españa sea capaz de defender que no haya recortes

común yo puedo asegurar que hasta donde he participado en debates hasta hace unos días justo hasta que hubiera este nuevo gobierno la posición política

español era defendida por unanimidad por cierto es defendida por unanimidad en todas las organizaciones agrarias y ganaderas que hay en el país

que no se podía aceptar un recorte presupuestario y que por lo tanto habrá que dotar de más recursos a la unión europea y los países tendrán que participar más

para que se pueda atender esta y otras necesidades o apuestas

efectivamente como se ha señalado aquí hay un nuevo gobierno ha habido varias apelaciones a ese nuevo gobierno me parece muy bien esto es un reconocimiento de que ya hay nuevo gobierno

que defienda las ayudas que hay en la política agraria común que se mantengan y que este parlamento salga en su defensa
y por lo tanto contribuya a apoyar esa posición en la política europea muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

dije yo que no porque quería no han dicho la segunda parte porque quería un mínimo común

no era el gobierno el que hablaba era un miembro del partido nacionalista vasco del grupo parlamentario yo ni he hablado con el gobierno de esto se lo puedo garantizar ni he hablado vieron

bien eso se lo puedo garantizar porque yo quería un mínimo común y de hecho

pero que sabía que a la señora lópez de ocariz no le iba a gustar tanto y yo creía quería

para la defensa de la agricultura por unanimidad y si ustedes presentaban una demanda que a mí me interesa mucho y que la he dicho en el texto y que el otro día lo dijo la señora tapia como es

me gusta pero estoy sacando a un grupo del sistema y yo lo que pretendía precisamente era tener el mínimo común de cosas

y recuérdelo vaya usted a la grabación mañana o pasado que ha dicho miren ustedes

el parlamento vasco muestra su apoyo al sector agrícola como diciendo con el apoyo no nos vamos a ningún sitio sabe cómo empieza la suya el parlamento vasco

insta al gobierno vasco a que en colaboración con las diputaciones avancen en desarrollo de políticas la suya dice el parlamento vasco insta al gobierno a que trabaje de forma coordinada con otras administraciones

la demanda españa y luego está la investigación actualizada que nosotros también tenemos la de eusko ikaskuntza a ver no son dos modelos agrarios diferentes y luego no le entiendo a usted no le entiendo a usted lo del forestalismo

primero primero los forestales son sector primario le guste más o menos y el pino también

no sé qué manía tiene no sé por qué quiere sacarlos del sector primario no sé por qué tacha a forestalistas no sé por qué dice que yo en nombre del gobierno le he colado

yo quiero a los forestalistas creo en los forestalistas y creo que hacen una gran misión los forestalistas ahora

un problema suyo no es mío y además no conoce muy bien el sector forestalista sabe cuál es la superficie media de un propietario forestal en euskadi

esa es la superficie media de un propietario forestal en euskadi no estamos hablando de grandes propietarios con miles de camiones no no

el sector del pino está teniendo un problema muy serio porque no sacan pino porque no da

y habrá que gestionarlo también no le demos mayor importancia pero en este país se producen alimentos y se produce madera que también genera riqueza en el medio rural

vuelvo a insistir yo venía con animus apaciguandi creo volveré a insistir que creo que merece la pena

toda la sociedad vasca es responsable también cada uno en su grado

salga a que haya renovación a que haya jóvenes que se incorporen

a vuelapluma el modelo es distinto yo cuando he hablado de que en cualquier sitio del mundo se puede producir

era un recurso digamos un recurso literario especulativo para intentar explicar lo que pretendo

hay sensibilidad social para sentirnos país que exista agricultura que se mantenga más allá solo del know how sino para producir de verdad alimentos